martxan jarriko dena uste dut guztiontzat onuragarria izango dela a día de hoy el turismo como se nos recordaba ayer creo a través de una comparecencia en la prensa de la consejería para dar cuenta de un informe

como una amenaza por la mayoría de la sociedad ni se tiene la conciencia de que exista un exceso de turismo en este país y eso es así básicamente porque no existe

un germen de problema como hablábamos en la interpelación en la que estamos llegando cerca del punto de saturación tenemos que mantener

que pueden conducirle al éxito que son el de una oferta de calidad diferenciada con personalidad eso está en las antípodas de la ilegalidad de la oferta clandestina de la masificación y por tanto entendemos que esta regulación a la que hoy se le va a dar un impulso y este avance hacia una oferta

reguladas y dentro de la legalidad va a ser también un elemento que contribuya a mejorar una oferta turística propia y diferenciada sostenible y con una personalidad propia como decía no es un problema el turismo en el conjunto del país es una actividad económica complementaria pero sí pueden haber zonas en las que hay que estar especialmente atentos a que no se convierta en un problema gaur abiatzen garen bidea edo jarraipena

sí buenas tardes gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señor casanova decía usted en la interpelación

da instrumentos jurídicos para dar respuesta a la realidad de las viviendas de uso turístico instrumentos jurídicos para evitar la masificación del turismo jurídicos para evitar la oferta ilegal para evitar que no se paguen impuestos en el desarrollo de una actividad económica

instrumentos jurídicos para evitar la proliferación indiscriminada de este tipo de viviendas

todo esto dice usted que tenía la ley qué ley aprobó usted señor casanova nada de esto está en la ley nada de eso por eso pide usted

nada de eso estaba en la ley y por eso algunos no votamos a favor de esa ley señor casanova lo siento como le decía

a este gobierno le toca desarrollar esos instrumentos jurídicos

con las teclas más certeras porque hay experiencias ya de regulaciones de este aspecto en todo el mundo en españa en europa

en todo el mundo están intentando regular y usted sabe que no es fácil porque como dice usted si tuviesemos esos instrumentos jurídicos en la ley se estarían aplicando pero como no están hay que desarrollarlos

diría yo a los que se enfrentan estas nuevas formas de alojamiento

en algunas de las figuras ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico

en esta actividad y por eso resulta tan complicado

de muchas comunidades autónomas de nuestro entorno donde implantaron una regulación y hoy están modificando porque realmente no es fácil

y aquí hay dos administraciones importantes por un lado la comunidad autónoma que tiene que hacer los decretos pero por otra parte los ayuntamientos con sus ordenanzas y otras cuestiones que les afectan transversalmente pero que tienen que colaborar por lo tanto

básica para el desarrollo de esta ley no se acordó de los instrumentos jurídicos por lo tanto hoy estamos aquí efectivamente para eso

solventar esas cuestiones que se quedaron en el aire en la aprobación de hace once meses de esta ley y cuál debe ser el papel de la regulación desde nuestro entender pues dar una solución a una actividad económica que cumpla con todos los requisitos igual que otra actividad económica pero además debe

que los núcleos urbanos no vean alterado el mercado de la vivienda en alquiler que se mantenga el número de hogares habitual de cada entorno

ese equilibrio mantenerlo y eso no es fácil por lo tanto hay un trabajo importante y eso desde luego no creo que sea cuestión de prisas y de urgencias creo que se requieren unos elementos de colaboración entre administraciones muy importante

no tendremos que caer en esos errores y ver aquellos que sí están dando resultados

y yo señor casanova que me decía que este informe me hubiese gustado tenerlo este diagnóstico previo a la tramitación de la ley de turismo y haber podido enfocar ese proyecto desde un mejor conocimiento y haber

de inmediata aplicación con la ley claro para haber sido eficaces pero usted no quiso y tenía una llave muy importante y no quiso entonces de qué se queja tiene una mala conciencia de haber aprobado esa ley si realmente herramientas yo creo que un poco de eso sí tiene y luego le decía al señor consejero que ya llega tarde

nadie es más responsable que usted en esta cámara por lo tanto creo que hay que trabajar mucho que

pedía usted que se haga un censo de viviendas clandestinas le decía lo de clandestino

el que no se detecta el que no lo conocemos el que no lo vemos luego están los irregulares que son los que afloran y sí que hay datos de viviendas que afloran yo

de viviendas clandestinas no he visto ni un solo dato porque clandestino es lo que no se conoce entiendo yo

un informe de viviendas clandestinas si en el momento que lo detectamos ya deja de ser clandestino será irregular

y habrá que invitarle a darle un plazo para que se

yo creo que en la tramitación del proyecto de ley se podía haber profundizado en muchos aspectos importantes de aplicación directa y creo que

tenían mucha prisa mucha urgencia y como dicen en mi pueblo

nosotros hemos presentado una enmienda que podíamos haber presentado con más puntos porque mire hay muchas cosas que se pueden hacer en esta área

cómo incentivan en algunos sitios a los propietarios de estas viviendas para que se incorporen a regularizar su situación

casanova creo que la ley de turismo hubiese sido mejorable sustancialmente en su tramitación con una tramitación normal ordenada que hubiesen primado los criterios sobre las urgencias que hubiese primado

y que ahora nos toca de alguna manera remediarlo a este gobierno que no participó en la tramitación arreglarlo y que entre todos con buena voluntad conseguiremos de alguna manera regularizar esta situación que de hecho es muy importante es un movimiento una actividad económica que está en todo el mundo que está aquí que ha venido para quedarse que tenemos que tratar que esté ordenada y que también

a que colaboren en que esto sea una actividad económica regulada que nos dé una parte de servicio del sector turístico y que lo veamos como una normalidad no como algo que nos agrede como se está viendo ahora nada más muchas gracias

sí gracias presidenta buenas tardes de la moción presentada

yo creo no equivocarme si concluimos que es un interés común la aplicación de la ley de turismo de euskadi que aprobamos el año pasado de forma rigurosa y efectiva

cómo se es más eficiente para lograr el objetivo entre quien tiene la responsabilidad de la gestión en este caso

la acción de gobierno y en esta ocasión creo que podemos felicitarnos porque hemos podido llegar a un acuerdo porque creo que además ese acuerdo es razonable para todas las partes

de turismo comercio y consumo comparte con el proponente de la iniciativa el objetivo de controlar el fenómeno de las viviendas de uso turístico no solo para hacer cumplir la ley que también sino para evitar que genere problemas en el uso

el fenómeno de las viviendas de uso turístico se ha desarrollado en un espacio de tiempo muy corto muy breve y lo compartimos con otros muchos destinos turísticos aunque en menor dimensión y a partir de las previsiones de la ley de turismo es preciso enfrentar la cuestión de las viviendas y habitaciones de uso turístico para asegurar un desarrollo del turismo un desarrollo urbano también sostenible asegurar una calidad un estándar de calidad y erradicar la oferta

política turística integral y además eficaz que es de lo que se trata la moción que planteaba bildu no podíamos apoyarla en un principio tal y como estaba planteada porque proponía la elaboración de un censo de la oferta

en un plazo de dos meses y esta cuestión se manifestaba además de ineficaz se manifestaba como un hecho

de cumplir por eso damos especial valor al hecho de que hayamos podido acordar para satisfacer la inquietud del proponente la realización de un estudio que permita establecer una estimación ajustada de la oferta clandestina de viviendas de habitaciones de uso turístico así como su zonificación de tres meses la enmienda que hemos logrado acordar con un amplio consenso entre los grupos políticos contempla yo creo que lo principal que es un plan de acción un plan de acción en el que el departamento de turismo comercio y consumo ya viene trabajando y además que viene determinado por una serie de pautas que yo creo que son esenciales y fundamentales

respetando las competencias municipales en la definición de los usos de suelo y gestionando

la sensibilización a los ayuntamientos sobre la importancia de tener una ordenanza específica que regule la implantación de este tipo de alojamientos

es el asunto nuclear de toda esta cuestión el asunto

respecto a las viviendas y habitaciones de uso turístico y dada la importancia del registro de empresas de actividades turísticas lo que se hace evidente es la gran necesaria campaña de información que ponga en conocimiento de las personas físicas o jurídicas titulares de este tipo de alojamientos a qué

la obligatoriedad de darse de alta en ese registro y dónde tramitar la declaración responsable evitando así que el argumento del desconocimiento o la ignorancia pueda ser un cauce para quienes pretende o pudieran tener la intención de hacer fraude de ley

sepa que puede ejercer su derecho de denuncia ante la administración turística de euskadi si lo considerara necesario cuando haya tenido conocimiento de la existencia de ese tipo

los decretos reguladores de viviendas y habitaciones de uso turístico que con toda probabilidad estarán finalizados este mismo año y yo creo que ese es un elemento una pieza clave de todo ese asunto debemos tener en cuenta que hasta mayo

y que en tres meses su número había aumentado en quinientos sesenta unidades

del cincuenta por ciento respecto a los seis meses anteriores a los seis meses precedentes y de ese número de viviendas de mil quinientos sesenta y tres en todo euskadi ochocientos veintiséis estaban

sin embargo estando clara la necesidad la imperiosa necesidad de tener un registro de actividades

también es preciso tener en cuenta la casuística de la oferta ilegal o clandestina cuya plasmación en un censo es más que difícil porque la oferta de viviendas que se anuncia

o no se conoce al titular de la vivienda o no se conoce ni siquiera la dirección de las viviendas

el registro de empresas de actividades turísticas sigue acumulando altas mes a mes

está concentrada en algunos puntos en algunas zonas muy concretas aunque es verdad una oferta clandestina no cabe por tanto hablar de un fenómeno de clandestinidad generalizado en euskadi aunque ello no significa que no se deba efectivamente atajar

a que establezca acuerdos con las asociaciones y plataformas comercializadoras de este sector para gestionar de forma ordenada esta modalidad alojativa para que se elimine la oferta

ayudará el estudio estimativo de esa oferta clandestina

con las haciendas forales porque compartiendo la información con este tipo de instituciones con las haciendas los titulares que consten en el registro van a procurar unos ingresos fiscales que van a redundar en beneficio también de la ciudadanía y por otra parte se facilita la oferta ilegal o la llamada clandestina

algunas de ellas que ya están en marcha es que ya se están realizando por parte del departamento de turismo comercio y consumo tienen que dar como resultado

a través de las viviendas y habitaciones de uso turístico como una actividad que se ajusta a las necesidades del sector y en perfecta armonía con las ordenanzas municipales de forma que esa actividad se ejerza con total transparencia y en beneficio de un desarrollo sostenible del turismo en nuestros pueblos y ciudades

que habíamos perdido un año desde la aprobación de la ley porque no teníamos

se está trabajando desde el primer momento en ese tema como digo en este año dos mil diecisiete tendremos ya seguramente con toda probabilidad los decretos listos y aprobados

creo que esa problemática de que parece que no se está haciendo nada no es cierta por tanto

público y notorio que desde la consejería se ha estado tratando con los ayuntamientos con el propio eudel en el trabajo de esa coordinación de ordenanzas municipales que en definitiva son las que

la realidad porque una cosa es cuando una actividad se traslada al registro

por ejemplo el hecho de tener una vivienda en un segundo piso

digamos que no contempla de verdad cuáles son las viviendas que deben de estar perfectamente ateniéndose a la ley registradas finalizo valorando

conseguido gracias a las aportaciones realizadas también por los grupos enmendantes también agradecer

de la iniciativa su disponibilidad a llegar a un acuerdo y por último por si sirve por el tema de no enfrascarnos a veces

clandestino que se efectúa sin los requisitos exigidos por una disposición legislativa

centro de atracción y turismoren bulegora eta han jartzen zenuen

y es una revolución que abraza a las nuevas tecnologías y como decía usted bien señora lópez de ocariz es una realidad que ha venido para quedarse es consecuencia de la digitalización y han surgido de una manera tan rápida y se siguen desarrollando de una manera tan rápida

y dependiendo de diferentes instituciones por cierto que satisfaga mínimamente a todas las demandas y a todas las partes implicadas y ya en el plano

en concreto de hace cinco años y que han quedado completamente desfasadas porque la situación no es la misma siempre en relación a este asunto

pero no ya solo el gobierno vasco o el ayuntamiento de donostia o tal diputación vayan ustedes a la propia unión europea y analicen que textos están aprobando

la última la resolución del quince de junio de parlamento europeo si la han leído

es muy interesante todo esto necesita una regulación eso nosotros lo tenemos claro porque más allá de la economía colaborativa que se ha tratado en

yo creo que no en esa dialéctica entre intercambio comercial versus colaboración todo esto de los pisos turísticos

o una economía del acceso es decir que va bastante más allá de una colaboración más o menos puntual entre particulares que no tiene ánimo de lucro el parlamento europeo en esa resolución a la economía colaborativa que trata de discernir las diferentes actividades la define como economía colaborativa con un propósito social bueno esto

una cosa completamente diferente en la medida en que se produce una profesionalización y en la medida en que de por medio existe un ánimo de lucro por tanto

que tenemos encima y que efectivamente va a seguir y va a seguir desarrollándose plantea paradigmas nuevos donde antes había una fábrica o un taller

donde antes habían trabajadores ahora hay usuarios productores donde antes había jefes

y donde antes había salarios ahora existen ingresos fluctuantes bueno yo estoy convencido de que en el futuro

se convertirá en plataforma yo creo que es un proceso imparable

la necesidad como dice el propio parlamento europeo y como creo que es la voluntad de todos nosotros incluido por supuesto del gobierno vasco de poner orden

esta nueva tipología de economía de la plataforma o economía digital

y que escapa a toda una serie de reglas de la ordenación de la economía como pueden ser normas laborales cumplimientos fiscales y protección de los consumidores

en más de una ocasión que los mercados funcionan bien si son regulados los mercados desregulados o no regulados provocan injusticias y desequilibrios inasumibles estamos de acuerdo este nuevo fenómeno tenemos que fomentar la innovación regulatoria también con un cambio de mentalidad quizá acerca de las leyes y de las normas

debemos saber gestionar la transición y la coexistencia de esta diversidad de modelos productivos en cada uno de los sectores afectados pero

y evitando abusos y consecuencias no deseadas bueno yo creo que ese es el espíritu con el cual trabajando el gobierno vasco y el departamento de comercio turismo y consumo y también es el espíritu de la proposición no de ley que hemos pactado porque entre otras cosas creo que el objetivo evidente es

yo creo que no estamos de acuerdo ninguno en eso está trabajando el gobierno vasco y para ello lo que pedimos y está haciendo el gobierno vasco es establecer una colaboración entre las instituciones públicas

la protección de datos establecer canales de colaboración interinstitucional sobre todo con las haciendas forales y los ayuntamientos para que estos últimos por ejemplo actúen desde la perspectiva de la ordenación urbana

que se han dado en otras ciudades del mundo con las entidades privadas del sector con las llamadas plataformas para intentar llegar a acuerdos de modo y manera

evitar atajar este tipo de actividad clandestina le pedimos al gobierno vasco también que haga un estudio porque

un censo suena a tener digamos en su localización el nombre y apellidos de quienes está esa actividad igual es una cuestión terminológica

pero bueno evidentemente el gobierno vasco sabe aproximadamente el número de pisos clandestinos que existen y eso lo puede incluso

lo difícil y lo complicado de ahí determinadas medidas y la colaboración institucional también y también la colaboración de las propias plataformas

saber exactamente quiénes son identificarlos y en su caso ponerles la sanción correspondiente también

para paliar este problema y si no podemos preguntar eso a diferentes ayuntamientos y finalmente las campañas informativas donde muestra yo creo que el compromiso claro y tajante de este gobierno por atajar este problema

y no será la última vez seguro que hablemos de esto porque esto es algo dinámico pero pensamos que estamos en el camino y el gobierno está en el camino de

buenas tardes a todas las parlamentarias debatimos hoy sobre la propuesta de eh bildu en relación a la situación actual

para uso turístico en euskadi una cuestión que debido a la falta de control y de previsión sobre los flujos turísticos así como la apuesta del gobierno por ofrecer el territorio

tradicionalmente asociados a la apuesta sin planificar por el turismo de masas preguntemos a las vecinas de los cascos históricos de donostia o de bilbo

afecciones directas en su vida como consecuencia del turismo es ahí donde es pertinente preguntar puesto que quienes no viven de forma diaria esta realidad difícilmente

puede ser considerado algo problemático el turismo por supuesto es una fuente de riqueza económica sí pero también social simbólica y cultural

de las diferentes dimensiones que tiene poner el foco de los esfuerzos solo en la primera de sus dimensiones como saben desde hace mucho en ciudades de todo el mundo supone reforzar un modelo cuyas consecuencias negativas son bastante visibles el tema que hoy nos ocupa el auge masivo de pisos turísticos en las ciudades vascas ha tenido como consecuencia que muchas viviendas

al alquiler turístico lo que a su vez está provocando en primera instancia el encarecimiento de los precios

como para compra y por tanto también la menor oferta de pisos para vivienda permanente

de nuestros pueblos y ciudades al albur de las distintas necesidades de una población estable o de una población estacional y cambiante

dentro del sector turístico en euskadi no podemos seguir promoviendo un crecimiento cuantitativo basado en los números y en las cifras obviando las consecuencias preocupantes que este empieza a tener ya en nuestras ciudades un turismo

ha demostrado tener consecuencias nefastas en otras ciudades como barcelona de cuyo ejemplo deberíamos tomar nota en más de un sentido nosotras apostamos por el desarrollo de un turismo sostenible ordenado y responsable

en el viaje como aventura de descubrimiento de otras culturas con ritmos pausados que hagan compatible el hecho de visitar una ciudad y la vida de las vecinas de aquellos lugares indudablemente tienen un interés por ser conocidas y visitadas ya hay a nivel mundial existe una red de ciudades que apuesta por otro urbanismo y por otro turismo

ni obligando a emigrar a los habitantes de las zonas históricas no se trata como les comentaba de poner el acento en lo exclusivamente económico recordemos

de todo aquello mirando lo que está pasando en ciudades como barcelona madrid ámsterdam san francisco nueva york percibimos que estamos

estamos camino de convertir algunas de nuestras ciudades en un parque temático turístico que expulsa a sus vecinas y provoca

que podrían dar un valor añadido a nuestro territorio prefieran otros destinos donde el coste de la vivienda y de la cesta de la compra no supongan un esfuerzo tan desproporcionado

ante el incumplimiento de los criterios establecidos en la ley de turismo y la complicidad y la falta de control de las instituciones esperemos desde nuestro grupo que esto cambie y que se empiecen a tomar medidas nosotras defendemos las nuevas oportunidades de la economía colaborativa

las mismas pero no se trata de eso de lo que estamos hablando aquí en definitiva hablamos de un creciente sector especulativo

están dejando de ser alquiladas para vivir y pasan a convertirse en un nuevo tipo de hostales por ejemplo en el ayuntamiento de donostia se están barajando cifras un escandaloso setenta y cinco por ciento de pisos alquilados fuera de la normativa además una mayoría de estas viviendas se encuentra inmersa en la economía sumergida

por lo que hemos escuchado hoy está dispuesto a colaborar porque a nosotras

esta visión una situación preocupante estamos trabajando para presentar propuestas en todos los niveles administrativos

que ayuden a desbloquear esta situación tan perjudicial para el modelo de ciudad y de turismo que nosotras impulsamos donde las personas que habitan en ellas no se vean obligadas a irse donde el pequeño comercio local tenga un papel fundamental en los municipios de euskadi planteando soluciones a fenómenos nuevos

y donde la ciudad sea en sí misma un polo de atracción para otros sectores productivos puede que a usted señor retortillo le parezca exagerado según ha declarado

sin embargo no solo nosotras vemos indicadores suficientes de la

en algunos puntos de la comunidad autónoma vasca sino que numerosos expertos

si se continúa en esta línea con una postura de inacción y negación de la realidad otras ciudades con el mismo problema ya lo hemos comentado

que tienen las viviendas para uso turístico entre ellas las inspecciones in situ de los pisos

y la clausura posterior de quienes no la cumplen la declaración de zonas saturadas

para pisos turísticos en algunos barrios etcétera para abordar con rigor esta cuestión deberíamos tener datos y cifras concretas y actualizadas fruto de la elaboración de un estudio completo como se solicita en la enmienda de transacción

de los pisos turísticos y de los servicios de alojamientos de este tipo que están desarrollando su actividad al margen de la normativa vigente para abordar esta tarea

y trabajar con las diputaciones forales y con los ayuntamientos en estos últimos años se estima que hay unos ochocientos pisos turísticos más anunciados en

la principal web de plataforma de pisos turísticos y que ha crecido de setecientos

de dos años asimismo como ya he comentado antes las tres cuartas partes de la oferta

es ilegal paralelamente en donostia que es quizá el punto que suscita mayor problemática en euskadi

ochocientos de los mil quinientos pisos de euskadi pertenecen y por actuación del gobierno se han cerrado ciento veintiocho pisos turísticos ilegales en lo que va de legislatura significaría que cada vez que un piso turístico ilegal desaparece aparecen unos cinco más en la ciudad

debería preocuparse por el bienestar de las personas que habitan en su territorio la seguridad jurídica

a visitarnos y el cumplimiento de la legalidad de quien ejerce una actividad económica que afecta a los recursos que son de todas o dicho en otras palabras pensar más en el bien común y menos ponerse medallas en este sentido tenemos que trabajar y coordinarnos para que el turismo en euskadi sea inclusivo e integrador

ni expulse a nadie que sea acorde a todas las economías y bolsillos y que no ahogue la posibilidad del desarrollo sostenible del territorio y de otros sectores de la economía por eso valoramos de forma muy positiva y entendemos que esta moción es un buen punto de partida por lo que nuestro grupo

que han alcanzado y esperando que esta iniciativa

parte de muchas otras y que desde el consenso podamos trabajar entre todas para que el turismo en euskadi tenga en cuenta los derechos de la ciudadanía y no solo las ganancias económicas

voy a faltar a mi palabra ya que la señora lópez de ocariz se empeña en crear polémicas donde no debería haberla probablemente esté en su naturaleza sea como

elija un poco mejor sus argumentaciones porque es que la que se pone en evidencia es usted misma

la expresión oferta clandestina cuando es la definición que da la ley de turismo a este tipo de ofertas usted se ha leído la ley de turismo usted estaba allí yo la vi la escuché

presentó enmiendas para eliminarla de la ley enmiendas que fueron rechazadas por tanto usted sabe que la definición que da la ley es de actividad clandestina

cómo me puede reprochar que me dirija a un fenómeno en los términos en los que la ley define a ese fenómeno eso sí que es venir con ganas de discutir por cosas absurdas artículo veintisiete epígrafe sobre la actividad clandestina oferta ilegal e intrusismo profesional no voy a seguir leyendo pero es que oiga en varios artículos de la ley se define este fenómeno como actividad clandestina yo por tanto me refiero con ese nombre ya sé que usted

ustedes trataron que esta ley no saliera adelante y todavía es que

la conciencia tranquila de haber colaborado a aprobar una ley

del turismo está de acuerdo usted tiene la conciencia tranquila usted cree que el sector del turismo aprueba su participación en esta ley o su intento

usted tiene la conciencia tranquila ustedes fruto de su arrebato neoliberal no querían ningún tipo de regulación

se realizara en la absoluta desregulación y dicen que esta ley es una chapuza porque no da instrumentos

y los millónes de euros que ya están ingresando las haciendas forales en este concepto dónde estarían si no tuviéramos esta ley se imagina que a estas alturas

y una oferta clandestina que puede ser incluso superior es decir con varias miles de viviendas en oferta

con los vecinos se imaginan la que se habría liado si no existiera esta ley de turismo esta ley con la conciencia muy tranquila bueno esta mañana hemos hablado de la pitonisa lola

en todo momento como la máxima autoridad en cuestión de turismo de esta comunidad

usted no sé qué oiga la hizo el gobierno del pnv y ahora está gobernando el psoe yo hombre en cierto sentido me siento elogiado que me trate

de una persona que ostenta tan alta responsabilidad pero el gobierno la ley la hizo el pnv claro igual usted no se puede meter ahora con el pnv

entonces una ley que hace el pnv y usted solo me dirige reproches a mí

igual es que como son sus nuevos aliados no tiene nada que decirles

bueno señora como le decía elija mejor los temas y deje de hacer el ridículo

efectivamente de polemizar solo una aclaración no me refería a que fuera un año perdido por la falta de desarrollo reglamentario que entiendo que tiene sus tiempos y los reglamentos tendrán que hacerse

sí me refería a la existencia de unos instrumentos que de haberse activado anteriormente

viviendas registradas sino a un número mucho mayor si esto que estamos aprobando en junio de dos mil diecisiete se hubiera puesto en marcha motu propio por parte del gobierno en enero de dos mil diecisiete probablemente ahora estaríamos en una situación mucho más avanzada pero como le decía no es un ánimo de polemizar más vale tarde que nunca arrancamos

su actitud y si realmente hay una coincidencia en la voluntad de que este tema se le dé una solución pues adelante y ahí estaremos colaborando en lo que sea posible

garcía que aunque no forma parte de los firmantes de la proposición porque no

recalcar que estamos fundamentalmente de acuerdo con el discurso que ha realizado y
que ha realizado y entendemos también en ese sentido pues nos encontramos en el camino eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

señorías en primer lugar quería decir que según el diccionario de la real academia de la lengua

secreto y especialmente o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla por lo tanto señora corcuera es algo más amplio que lo que usted ha dicho aquí

cómo hay que aplicar el rigor de los términos que se utilizan señor casanova no tiene remedio su interpelación por tanto tenemos unos instrumentos tenemos una ley que quizá dentro de unos años tengamos que decir que no ha funcionado manda narices después de haberla aprobado ahora ya se está poniendo

si no la hemos puesto en marcha esos logros cómo se han conseguido si no la hemos puesto en marcha

no hay efecto de la ley y si no hay efecto de la ley

consejero con todo su equipo lo tiene que reglamentar tiene que hacer los decretos tienen que hablar con los ayuntamientos tienen que hacer las ordenanzas con eudel señor casanova todo por hacer pues claro y nosotros

claro perfectamente le he dicho lo que significa clandestino para que le quede claro porque yo creo que todavía no lo ha entendido

y a la portavoz del grupo podemos yo le diría que me encantaría

actividad del uso turístico de las viviendas y de otro tema que no hablamos pero que también hay que regularlo que nadie se atreve a tocarlo no esta comunidad autónoma ninguno las habitaciones de la vivienda habitual que ese es otro foco importante y que también hay que tocarlo por lo tanto

muy complicado pero hay ejemplos hay modelos que están funcionando y mire baleares reguló en el año dos mil cinco

de viviendas clandestinas por lo tanto

efectivamente pero como decíamos antes esta actividad ha venido para quedarse está aquí y entre todos tenemos que lograr que sea una actividad que aflore que se convierta en normal y que todas lo aceptamos

zurea da hitza sí con permiso presidenta

sí me gustaría aclarar porque no quiero que quede en la duda de la cámara cuando se ha intentado hacer la similitud por parte de la representante del elkarrekin podemos respecto al problema que significa el turismo en ciudades que no están preparadas para ello y ponía como caso

a mí sí me gustaría dejar muy claro que san sebastián tiene como ciudad un planeamiento absolutamente preparado para lo que es el desarrollo turístico

a través de su normativa urbanística que es una ciudad absolutamente equilibrada en cuanto a los diversos sectores económicos que le afectan y que por lo tanto es una ciudad que está en estos momentos percibiendo que puede existir un problema no tanto de saturación como problemas de regulación de estas viviendas y habitaciones de uso turístico y que por lo tanto

para evitarlo por tanto creo que en este caso no proceden ni las alarmas respecto a un fenómeno que como decían antes algunos

es muy reciente pero que no hemos llegado ni de lejos a tener los problemas de la dimensión que tienen otras ciudades en españa y en europa

es de poner en marcha y que ya se venía haciendo además comentaba el señor casanova

arranquen y se pongan en marcha y que la ley comience le he dicho antes señor casanova el tema

no viene de ayer no viene de hoy no viene de hace quince días ni viene de hace un mes soy testigo

de que el tema de la preocupación por las viviendas de uso turístico viene desde hace muchos meses y que por eso se está trabajando

empiezan algunas ciudades y algunos pueblos a ponerlas en marcha lo que hay que hacer es coordinar por lo tanto esto ya lleva tiempo no todas las medidas del plan de acción pero sí muchas de ellas por lo tanto creo

que de lo que se trata es de tener un desarrollo turístico sostenible en eso hay un verdadero empeño por parte del consejero y de su departamento y creo que esa es la línea

quién ha hecho más y quién ha hecho antes qué me parece que es bastante

plantear medidas que sean realizables y por eso le agradezco el hecho de no haber insistido en mantener el censo de las viviendas y habitaciones

como todavía no nos ha dado el bajón de azúcar porque acabamos de terminar de comer

a la señora lópez de ocariz yo tengo aquí se lo leo

que se efectúa sin los requisitos exigidos por una disposición legislativa

para intentar disipar en la medida de lo posible todas las dudas temores apocalipsis que puedan existir un extracto si me permite de una reciente entrevista al alcalde

que estoy completamente seguro que el consejero no solo lo ha dicho haya dicho exactamente lo mismo sino que bueno hace suyas donde le preguntan de este tema y dice

eso está claro pero no soy partidario de caer en exageraciones los datos comparativos con otras ciudades con las que a veces nos medimos de forma errónea

que la situación de donostia es buena y al alza pero todavía está lejos de escenarios de masificación que conocemos en otros lugares esto quiere decir que resulta más oportuno que nunca que la reflexión la hagamos ahora

y merece la pena que nos detengamos veamos cuál es nuestra realidad el horizonte al que queremos llegar qué efectos negativos podemos sufrir y cuáles queremos evitar hasta ahora nuestro interés era la atracción y la promoción pero hoy en día nuestro deseo es también

encuentre aquí un destino de calidad y una ciudad de verdad en la que viven y trabajan sus habitantes también tenemos sobre la mesa

la parte vieja estamos inmersos en el debate la planificación y el diseño de toda esta estrategia no sé si le tranquiliza

mala suerte pero bueno sigo manteniendo y creo que las pruebas

que la actuación interinstitucional del gobierno vasco del propio ayuntamiento más allá de la concienciación que ya existe

en los próximos meses se va a ver cómo desde la actuación y desde la acción

efectivamente a intentar atajar esos problemas que

insisto no hay que exagerar no sé si fue usted la que en un anterior debate puso el ejemplo de venecia pero venecia zu izan zinen jo haber venecia en su centro histórico tiene sesenta mil habitantes y recibe

pues necesitaría recibir para que los problemas se reprodujeran unos treinta millónes de visitas al año

legebiltzarkideok hay corrupción política en euskadi badago ustelkeria politikorik euskadin

badago ireki ditzagun begiak abramos los ojos de una vez sí sin duda alguna existe la corrupción política en euskadi

por parte de este parlamento y del gobierno vasco para acabar con esta lacra por supuesto

se han cumplido los mandatos de este acuerdo tres años después pues lamentablemente hay que decir que no que no se han cumplido

tender la mano para resolver un grave problema de nuestra sociedad

y muy particularmente un problema de los partidos que gobiernan esas instituciones pero que es un problema que nos afecta a toda la ciudadanía por qué

corruptas que hay partidos con problemas de corrupción zergatik esaten dugu gure herrian ustelkeria dagoela pertsona ustelak

porque la primera estadística pública sobre corrupción en euskadi señala que entre dos mil quince y dos mil dieciséis hubo veintiocho cargos públicos vascos procesados

al mismo tiempo tres más declaraban como imputados en el juzgado bi alkate kondenatuak izan ditugu eta hiru gehiago inputatu bezala deklaratzen

no lo vamos a hacer porque no es eso a lo que hoy venimos pero sí queremos citar algunos casos que son especialmente significativos para entender las medidas contra la corrupción

propuesta el caso de miguel un caso que afecta de lleno al partido nacionalista vasco en araba con veintiocho imputados el consejo general del poder judicial lo ha calificado como el mayor caso de corrupción de euskadi el mayor caso de corrupción de euskadi

en el que se investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos adjudicaciones a empresas no solo a cambio de comisiones ilegales sino que además eran empresas de amigos este caso se denunció en el año dos mil nueve la instrucción acumula

de este año dos mil diecisiete la presidenta de la audiencia provincial en araba decía y voy a citar literalmente ya me gustaría a mí que el juicio del caso de miguel comenzara mañana está previsto que comience

ocho años después de la denuncia ocho años después en el transcurso de estos años ha habido declaraciones de políticos no hablo tampoco de políticos cualquiera

que afirmaba que el pnv era ejemplar bueno esto también lo decía usted antes de quejarse amargamente de lo altas que eran las penas que pedía la fiscalía para sus ex compañeros de partido para ello también comparó las penas con las de urdangarin y con las de bárcenas

lo digo porque poco después se afanaba usted también en afirmar que aquí no existía ese tres por ciento

hoy no toca hablar del caso de miguel así que no voy a entrar a responder a estas afirmaciones

pero con ser isiltasuna mesedez el mayor caso de corrupción el caso de miguel no es el único

ha habido varios más también muy relevantes como el de bilbao air con una insultante lista de mariscada a costa de todos o el caso kutxabank en el que desde una caja semi pública semi privada se pagaron

falsas a un ex cargo socialista o el caso epsilon e hiriko con malversaciones de subvenciones públicas negociadas por el partido nacionalista vasco en madrid

por qué hemos propuesto lo que hemos propuesto por qué hemos traído aquí lo que hemos traído hoy aquí baina zeintzuk dira gure proposamenak zer da guk hona ekarri duguna

medios que los propios fiscales vascos han pedido una y otra vez una y otra vez son recurrentes las peticiones de medios materiales de personal especializado han dicho en más de una ocasión

facilita la impunidad de los delitos de corrupción la falta de medios facilita la impunidad de los delitos de corrupción

tienen más medios que la propia fiscalía algunos dirán que son declaraciones antiguas

saben qué han dicho en su última memoria anual la fiscalía vasca

la fiscalía de donostia está infradotada de personal se necesita incrementar la plantilla de la oficina de bilbao o reforzarla

se reitera la petición de la memoria del año anterior sobre la necesidad de incrementar la plantilla de la fiscalía de gipuzkoa el segundo punto que solicitamos en nuestra propuesta

o una fiscalía delegada especializada en este ámbito no digo nada nuevo si recuerdo que esta ya ha sido una reivindicación

aumentar los medios materiales y humanos con los que cuenta la ertzaintza para luchar contra la corrupción cuarto punto desarrollar al máximo la ley cuatro barra mil novecientos noventa y dos de la ley de policía vasca en lo relativo

permanentemente de tribunales y de la fiscalía pedimos expresamente que se creen oficinas judiciales en las propias sedes de la administración de justicia

por su implicación en la fiscalidad sexto a propuesta de eh bildu con los que compartimos una enmienda transaccionada pedimos

proponemos que se cree un censo público de personas y empresas condenadas por este tipo de delitos que se ponga a disposición de la ciudadanía

toda la información relativa a este tipo de casos y por último pedir a euskal irrati telebista nuestro medio de comunicación público el medio de todos y de todas

que dé un tratamiento informativo a los casos de corrupción en euskadi con la gravedad que efectivamente tienen este tipo de casos a veces resulta curioso ver que ocupan mucho más espacio las corruptelas en madrid

no digo que no sean ni más ni menos graves que las de madrid lo que quiero decir es que simplemente

no impera a veces en euskal irrati telebista bueno

pero he empezado hablando del caso de miguel un caso poco conocido por la ciudadanía a pesar de ser el más grave como he comentado antes tiene que ver algo con esto

tendrá algo que ver la falta de medios que tiene para realizar esta instrucción tendrá algo que ver la falta de la especialización en la fiscalía

un caso en el que veintiocho imputados a través de recursos son capaces de demorar el inicio del juicio con qué actitud

acuerdos incluso compartidos que están muy afectados por este tipo de casos de corrupción como el partido nacionalista vasco y el pse he dicho al comienzo que la nuestra era una mano tendida

no hay ningún tipo de atajos que esta lucha no es contra ninguna fuerza política no lo es solo es contra los corrupto por lo tanto necesitamos unir fuerzas entre todos y entre todas

ante esta lacra pie en pared señor latxaga que pasa por hacer un diagnóstico de la corrupción en euskadi

me dirijo al señor latxaga porque él junto con la señora castelo que está ahí

una cuestión inédita en esta cámara necesitamos saber como le detallábamos en la petición de la comparecencia del señor zelaieta

de este tipo de casos su tipología y su situación pero usted señor latxaga le pone un muro a hablar de estas cosas en este parlamento usted ha puesto un muro a la posibilidad de trabajar todas las fuerzas políticas

a su problema el de su partido fundamentalmente esto último quizás es una casualidad no por lo tanto

a todas las fuerzas que hay en esta cámara que mañana permitan con el voto en contra de la resolución del señor latxaga

están dispuestos a hablar de corrupción y están dispuestos a luchar contra la corrupción que mañana también demuestren no solo hoy sino que mañana también demuestren que están dispuestos a abrir las puertas de este parlamento para hablar de corrupción y no se vete ninguna a ninguna persona en este parlamento para que comparezca y haga un diagnóstico de la corrupción en euskadi hoy nosotros hemos remitido varias versiones de la enmienda transaccionada hemos incluido el orden de puntos

hemos incluido frases y términos cogidos literalmente de su propuesta de enmienda pero han respondido con un no

a las dos propuestas ni siquiera una propuesta de vuelta ni siquiera

no quieren que hoy este debate salga nada ustedes prefieren irse de rositas ustedes hoy vienen a enfangar el debate ustedes hoy lo que quieren es no

a sus alcaldes condenados y a su dirección alavesa imputada porque si hoy en euskadi

son estos presuntos delincuentes que he citado una pena quizás también casual que no hayan incluido estas cuestiones en sus pactos presupuestarios en madrid

seguimos apostando por la mano tendida seguimos queriendo saber por qué no quieren instar a e i te be a informar con más independencia a informar con más rigor a informar con más objetividad sobre la corrupción en euskadi queremos saber por qué no quieren que la ciudadanía conozca quiénes son los corruptos queremos saber por qué no quieren aumentar los recursos de la ertzaintza y la fiscalía para luchar contra este auténtico dolor social

dolor cívico que es la corrupción y queremos saber por qué ustedes con la sucesión de condenas e imputaciones a alcaldes de estos meses

los recursos con los que ya cuentan y no luchar lo suficiente contra la corrupción eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

de la primera de las corrupciones corruptelas legales aquella que se ejecuta con la ley en la mano

como delito esa que ha supuesto una de las razones que explica los procesos de privatización y externalización de rentables y eficientes servicios públicos para financiar en algunos casos a partidos políticos o sus fundaciones colocar a la clientela o colocarse o los tratos de favor que reciben algunas empresas que posteriormente

y responsabilidades institucionales pasan a copar los consejos de administración o esa corrupción legal que ha convertido el sobrecoste de las obras públicas en una costumbre en instituciones gobernadas por determinados partidos seguramente haya muchas más maneras de ejercer esa corrupción legal pero la verdad es que en eh bildu no estamos nada puestos en la materia así que disculpen si hay alguna de las fórmulas que no he citado que se me escapan de la segunda forma de corrupción de la corrupción ilegal estamos asistiendo en los últimos tiempos a un festival por todo lo alto en el reino de españa pero

circunscribe araba gipuzkoa y bizkaia así que me voy a centrar en ello

tenemos también el max center de barakaldo conocido o las oposiciones de osakidetza estos últimos con delitos y penas de cárcel ambos

de la sede de un partido que tiene representación en esta cámara en bilbao tenemos

hayáis oído hablar de la lonja de pasaia el caso pinosolo el caso telleria

el caso del museo balenciaga epsilon hiriko caso trama de miguel del que señor martínez no ha venido hoy a hablarnos así que yo tampoco voy a hablar de ello

o las prácticas irregulares que estos días hemos conocido de metrópoli

etcétera tenemos como ha recordado el señor martínez también en varias localidades y municipios de la comunidad autónoma vasca

en zamudio una ex alcalde condenada por corrupción en mallabia

muskiz ex alcalde condenado zierbena imputado

condenado en galdakao la ex alcalde y tres ediles condenados en elantxobe también por prevaricación derio el alcalde también imputado

y una lista muy larga que me han pasado que muchos casos sin ser corrupción ilegal

podríamos hablar de prácticas cuanto menos irregulares y dudosas por comentar algunas conocidas y que

lemoa y su choco clandestino con los puros tenemos el caso zarautz lur

que son campeones de europa en corrupción en todas las modalidades por cierto

baina guztiek dute gauza amankomun bat ez dira jokabide etiko eta ez dira jokabide moralak pero si hay tantos casos en la comunidad autónoma vasca

por qué no está la corrupción en los primeros puestos en el ranking de preocupaciones de los y las vascas es una cuestión que en el último estudio que ha hecho el gabinete de prospección sociológica del gobierno vasco dentro de los principales problemas de euskadi la corrupción aparece

por lo tanto está bastante arriba pero no es uno de los principales sin embargo si lo comparamos con los estudios

en el estado español la corrupción y el fraude es segunda causa de preocupación

y el desempleo a nuestro entender esto se debe por una lado

implementado en la sociedad vasca y por otro a que hay una decisión política de silenciamiento

y es lo que nos referíamos en el punto siete de la transacción que hemos firmado con el grupo elkarrekin podemos de instar a e i te be a que realmente

trate estos casos de corrupción con el rigor y con la gravedad

pero no solo en los medios y lo ha dicho el compañero de elkarrekin podemos mañana mismo en esta cámara asistiremos a un veto en la comisión de instituciones seguridad

a no ser que cambien las posturas a fin de que presentase un diagnóstico de la subrogación actual de la corrupción política en euskadi es un veto que viene dado como bien a señalado el señor martínez por parte del pnv y del partido socialista de euskadi muy sintomático de verdad y aún así

dato con ustedes azkeneko

el último deusto barómetro por cierto donde el acuerdo presupuestario de pnv pp no se valora tan positivamente como otros estudios o el acuerdo presupuestario en madrid tiene a más gente en contra que a favor en ese mismo estudio también se

y se pregunta crees que hay corrupción por un lado en el gobierno español el noventa y dos por ciento de las personas consideran que hay corrupción pero

consideran que hay corrupción en el gobierno vasco el treinta y cinco por ciento en las diputaciones forales y el treinta por ciento en sus respectivos ayuntamientos oso kezkagarriak benetan

egun on guztioi último punto de debate del pleno de hoy y del último antes de empezar el verano y yo venía a debatir una proposición no de ley que había presentado elkarrekin podemos con respecto a la fiscalía y a la situación de la fiscalía no venía a vender ningún libro pare ser que quien me ha precedido venía a vender el libro que querían hacer entonces yo la parte justificativa de lo que es esa proposición de ley original en la que usted ha dicho que nos ha tendido la mano

la bancada de eh bildu porque conmigo ni se ha cruzado ni un correo ni una llamada ni una palabra si usted pretende que hablar con los señores de eh bildu o los señores del partido popular o lo señores del pnv significa hablar con el grupo socialista está usted muy pero que muy equivocado por tanto no diga que ha tendido la mano ni ha buscado absolutamente ningún acuerdo usted lo que ha debido de hacer es

y a partir de ahí venir aquí a decir lo que usted quería decir porque poco le importaba que solvente o ponga medidas encima de la mesa pero bueno ese es un problema que tienen ustedes y que vienen repitiendo durante ya este tiempo de sesión parlamentaria en fin la propuesta que ustedes traían tenía su origen en la comparecencia en el año dos mil trece hace cuatro años

en sede parlamentaria en la comisión de justicia y que tenía además su justificación en la memoria del año dos mil doce de hace cinco años y en un apartado concreto que era el relativo

decían ustedes en su proposición esa que tenido el gusto de poder leer y trabajar que a pesar del acuerdo adoptado por mayoría en este parlamento en el año dos mil catorce

instituciones concernidas ha resuelto las carencias que se ponían de manifiesto y esto lo saben ustedes no se ajusta para nada a la realidad voy a partir mi exposición compartiendo una reflexión que se recogía en aquella memoria del año dos mil doce que es la que usted ha debido leer

para que usted se vaya también informando que tenemos tres memorias presentadas detrás de la del año dos mil doce y que es conveniente su lectura

hay que ser consciente lo decía el fiscal de la comunidad autónoma hay que ser consciente que el fenómeno de la corrupción no es puntual sino consustancial a toda

mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político y la dotación a la administración de justicia de medios materiales personales y normativos que permitan una respuesta punitiva real y eficaz atajar un fenómeno

como es el de la corrupción tiene que ser abordado con actuaciones de prevención administrativa y conciencia social resultando el último instrumento el del derecho penal la verdad es que todos compartimos o eso creo

para el beneficio personal o privado es uno de los problemas que preocupan a los ciudadanos y que ocupan a los grupos políticos

pero dicho esto yo no puedo permitir que se diga que nada ha cambiado desde el dos mil catorce hasta ahora porque siendo cierto que hay cuestiones que deben ser mejoradas hay margen de mejora en esta y en otras cuestiones resulta necesario resaltar lo recogido en la memoria del dos mil quince por la fiscalía de la comunidad autónoma

dice constatamos la confianza de las instituciones y particulares

en la remisión de causas relacionadas con fraudes económicos y en general con respecto a delitos contra la administración generalmente asociados a fenómenos de corrupción puesta en conocimiento que puede tener su razón de ser en la celeridad e impulso por parte de nuestra institución

de ahí puede ser también verdad la justificación que le extrañaba al portavoz de eh bildu que ha intervenido de por qué igual en euskadi

en el resto del estado porque lo decía el propio fiscal en la comparecencia existe confianza de los ciudadanos en la actuación de la justicia en la actuación

para que la fiscalía quiera destacar en su informe esa confianza ciudadana

en los delitos relacionados con la corrupción ustedes han hecho aquí una lista desde luego toda esa lista de actuaciones

que están siendo investigados y actuados por el ministerio fiscal es que cuando vienen aquí parece que son casos impunes algo funcionará

pues en fin y es cierto y ustedes lo saben que desde esa aprobación en este parlamento en comisión

que se han producido refuerzos de personal en las oficinas de estos territorios que se ha avanzado en la formación específica de fiscales

a los requerimientos de jueces instructores tribunales y fiscalía y que existe margen de mejora no es algo que lo diga yo ni que lo diga usted sino que lo dice

y que dijo que aún reconociendo que se habían producido modificaciones legales que habían producido una agilización extraordinaria de la tramitación de las diligencias de investigación porque se ha limitado a seis meses la duración máxima de las mismas y que eso

seguían persistiendo algunas disfunciones y nos mencionó en concreto dos el sistema informático que por cierto no afecta solamente a la tramitación de este tipo de delitos

de jueces tribunales y fiscalía de la policía judicial aunque también nos matizó a preguntas precisamente de elkarrekin podemos que ello no podía servir de excusa a la fiscalía para realizar bien su trabajo y que desde luego estaban satisfechos con lo que realizaban posteriormente y a requerimiento de los grupos

a la creación de la figura del fiscal delegado para delitos económicos y relacionados con la corrupción los socialistas saben ustedes que gestionamos la consejería de justicia

para la modernización y mejora de la administración de justicia para el propósito del desarrollo de un plan de impulso de la tramitación electrónica de los expedientes judiciales

el refuerzo de la calidad de formación de fiscales jueces magistrados y letrados entre otras cuestiones todo ello orientado tal y como pusimos de manifiesto en un servicio público de justicia de calidad que sea apreciado por los ciudadanos los socialistas compartimos mucho de los puntos de la resolución que plantea la iniciativa presentada

a través de una formación continua específica que les permita una mayor agilidad en la comprensión y en la tramitación de las diligencias de investigación de estos

delictivos el recurso a peritos especializados ya se realiza y se podrá seguir realizando si así se solicita pero creemos que la línea de trabajo debe estar en facilitar una formación específica necesaria a los que son los verdaderos protagonistas de la investigación es decir a los y las fiscales conoce también el proponente porque no los explicó con todo lujo de detalles incluso histórico el señor calparsoro que según la normativa vigente la dependencia de la unidad de la policía judicial

y no orgánico siendo esa la dependencia funcional la única que el marcó como una línea de trabajo a mejorar por tanto no comprendo o no entiendo cuál es el motivo que tienen ustedes para ir más allá de lo que el propio representante de la fiscalía nos marcó como actuaciones posibles al responder a una pregunta que le realizó su portavoz en aquel momento el señor uria de qué podíamos hacer desde el parlamento para coadyuvar a los fines de la fiscalía es por eso que los socialistas y nacionalistas hemos presentado una enmienda de totalidad que pretende recoger las cuestiones donde creemos que hay margen de mejora

no solo en materia de corrupción sino en todos los ámbitos en los que actúa según lo que se nos manifestó como necesidades por parte del señor calparsoro así cuatro son los puntos que recogemos la solicitud al gobierno de españa para la creación del fiscal delegado para delitos económicos relacionados con la corrupción en euskadi para que se dote los medios materiales y personal necesarios para mejorar el funcionamiento y la eficacia en la lucha contra el uso ilícito

que se implementen medidas que doten de una unidad de policía judicial con dependencia real y funcional de la administración de justicia y un último punto para aceptar la colaboración

en la celeridad en la investigación de las denuncias pero tristemente y pese a que compartimos el objetivo

ni parece ser que le interesaba llegar a un acuerdo con el partido socialista y simplemente y para que no me quede

hay algunas cuestiones que mezclan aquí de una forma yo creo que totalmente demagógica

vienen a contar no aquello de lo que trata su iniciativa sino del libro que nos quieren contar y vienen mezclando las cosas con vetos que por cierto se debatirán mañana

de por qué consideramos que no es necesaria esa comparecencia aquí

este parlamento aprobó con los votos a favor de los grupos socialista popular nacionalista y upyd

que se relea las comparecencias que tuvieron lugar en la comisión de instituciones seguridad y justicia los días doce de noviembre y dos de diciembre del dos mil trece donde se hacía referencia a la memoria de la fiscalía del ejercicio del dos mil doce y que dio lugar a aquella iniciativa a la que usted ha tomado como base

una de las fiscales en aquella comparecencia manifestó que este año se pidió este apartado específico

necesidad perentoria de aplicaciones informáticas prioridad de fiscalía acceso a las bases de datos de la información mercantil

y que se potenciase las unidades de la policía judicial en esas mismas comparecencias para explicar la memoria escrita del dos mil doce a las que yo pude asistir como miembro de esa comisión el fiscal superior de justicia confirmó que esas peticiones concretas habían sido atendidas en partes o iban a ser por los distintos departamentos

entre fiscalía y el gobierno vasco calificándola como coordinación y colaboración muy positiva literal la relación con el gobierno vasco es muy buena y muy positiva hala ere eskaera horien

besteko proposamen bat dicen que más de tres años después ninguna de las instituciones concernidas en la citada iniciativa ha resuelto estas graves carencias

lógicamente los recursos no son ilimitados y siempre queda margen de mejora pero primero en relación a los medios personales se consolidaron los refuerzos existentes por encima del número de plazas de la plantilla orgánica y se sigue dotando a la fiscalía de más medios personales nunca suficientes eso sí

destina ocho millónes de euros para inversiones en la nueva sede de la fiscalía

tanto el departamento de seguridad como el de justicia están realizando grandes esfuerzos

para mejorar todos los sistemas informáticos mejorando así la eficacia policial judicial y fiscal también se les ha facilitado el acceso solicitado a las bases de datos de la información mercantil y se ha firmado un convenio para que los fiscales puedan acudir a los cursos de formación que hasta ahora estaban reservados a funcionarios de la administración autonómica y actualmente

y no solo supone una mejora cuantitativa duplicando el número de efectivos destinados en estas unidades sino también cualitativamente ya que desde el plan estratégico horizonte

y coordinadamente realmente señor martínez puede decir que en estos tres años no se ha hecho nada que no se han resuelto esas graves carencias a lo que se refería en la iniciativa que ha tomado de base

era una cortina de humo para hablar de otras cosas como luego veremos además en estos últimos años también se han tomado otro tipo de medidas en euskadi en contra de la corrupción pública le recuerdo la aprobación por el gobierno vasco del código ético y de conducta de los cargos públicos y personal eventual de la administración general e institucional de euskadi

y de los conflictos de intereses de los cargos públicos el proyecto fallido de ley transparencia

y que se intentará aprobar nuevamente esta legislatura no obstante a pesar de no contar con una ley aprobada

transparencia internacional y se han dado otros pasos por ejemplo relativos a contratación perfil de contratante etcétera

no se ha quedado en el dos mil catorce sino que mira al futuro y el cual me imagino que conocerá y no le voy a leer pero mírese los compromisos con la transparencia recogidos la formación y adaptación profesional de la ertzaintza y el sistema judicial moderno

después de eso después del dos mil trece también anualmente el fiscal superior

y más recientemente el siete de febrero de este año el fiscal superior de la comunidad autónoma compareció en la comisión de trabajo y justicia para explicar la memoria de la fiscalía correspondiente al ejercicio dos mil quince última presentada en este parlamento y yo no recuerdo haber escuchado de su boca

en ese memoria dos mil quince se hablaba de los delitos económicos que también tenía un apartado específico

de doce áreas y donde se afirma que la relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad es fluida en los tres territorios

que realiza un trabajo satisfactorio hori dela eta

ez jarraitzeko y llegamos al punto clave de su iniciativa creen que es de interés político y social volver a abordar esta cuestión que genera

evidentemente el tema de la corrupción política es un tema preocupante y que genera gran indignación ciudadana y justificada por cierto en muchos casos

tiene claro que hay que poner todos los medios posibles para acabar con la corrupción política y que hay que adoptar medidas contundentes contra los corruptos pero también que hay que respetar la presunción de inocencia

y establecer todas las garantías procesales necesarias para evitar adoptar medidas injustas ilegales irreparables y desproporcionadas contra una persona inocente como alguna de las iniciativas que plantea eh bildu en su enmienda

en este sentido hace escasos quince días se presentó la memoria dos mil dieciséis de la comisión ética pública

que hasta la fecha todas las instrucciones judiciales cerradas en las que había hasta siete cargos públicos del gobierno investigados han sido todas archivadas por los propios tribunales y en ninguna denuncia ha llegado a la fase de juicio oral por lo que la comisión hace una recomendación

en la exigencia de medidas preventivas a las y los cargos públicos porque podría acarrear perjuicios irreparables a la imagen de las personas afectadas por lo tanto criterios y gente pero prudente porque del resarcimiento en estos casos pocas veces he oído yo hablar en esta cámara a algunos grupos hori esanda

emaitzek eta epaileek fíjese se ha mencionado antes en el último barómetro del cis

y las españolas con un cuarenta y dos por ciento a diecisiete puntos del primer asunto por el contrario según el último sociómetro en euskadi

ocupa la posición número nueve con un cinco por ciento a muchísima distancia del primero que es el empleo setenta y cuatro puntos y luego están los datos reales de personas condenadas firmes por delitos relacionados con la corrupción pública a pesar de los reiterados intentos de unos y otros por la vía de la denuncia o la puesta en conocimiento de la fiscalía

decía que no merecía la pena ni hacer mención pero bueno aquí se ha mencionado a dos alcaldes condenados

el señor estarrona ha hecho un cóctel aquí de imputados incluso se ha mencionado casos que están archivados ya judicialmente el otro día una parlamentaria de su grupo hablaba de que un político tiene que tener honestidad y yo le puntualizaba que además de

responsabilidad pues usted no ha tenido ni honestidad ni responsabilidad volviendo a mencionar aquí casos que están archivados judicialmente incluso se ha permitido hablar de corrupción moral en el segundo turno

básicamente buscando réditos partidarios pretenden extender la sombra de la corrupción de españa a euskadi pero ya ven que aquí no tiene mucho recorrido por ese camino habla el señor martínez de mano tendida yo diría mano extendida ya ha dicho habrán preferido irse de rositas cosa que no queríamos entrar

ha hablado del denominado caso de miguel el mayor caso de corrupción de euskadi antes lo fueron los comedores escolares

veremos cómo terminan esos juicios dejemos trabajar a la justicia que es lo que usted está pretendiendo entrando ya a la propuesta

podemos estar de acuerdo si bien es una decisión que corresponde al gobierno de españa de quien depende la fiscalía general del estado y que si bien creó la fiscalía general anticorrupción en el año mil novecientos noventa y cinco hasta ahora veintitrés años después no ha visto la necesidad de crear una delegación en euskadi y por ello así lo reflejamos en el primer punto de nuestra enmienda de totalidad respecto al segundo punto

los medios materiales dedicados por la ertzaintza contra los delitos de corrupción así como aumentar el número de agentes dedicados a su investigación con la formación y cualificación precisas y cómo se hace esto señor martínez yo creo que con dinero con recursos económicos

de seguridad ustedes presentaron cincuenta y tres enmiendas en materia de seguridad cincuenta y uno planteaban minoraciones de partidas por importe de más de once coma cinco millónes y únicamente dos planteaban aumentos y no precisamente para atender

por favor señor martínez dónde en qué enmienda o enmiendas presentadas cinco semanas antes de esta iniciativa se planteaba por elkarrekin podemos

contra estos delitos y aumentar el número de agentes con la formación y cualificación precisa

de los gastos corrientes de la academia vasca de policía y emergencias que es donde se requiere esa formación específica principalmente cómo casa esto porque el plan de formación de arkaute indirectamente y enmendados por ustedes prevé la realización
de cursos de especialización de actualización y amaitu mesedez zorrilla jauna y perfeccionamiento de investigación criminal y de inteligencia para un total de setecientos setenta y cinco agentes

propuesta de aumentar el número de agentes con la enmienda que transaron el pasado diecinueve de junio con eh bildu para intentar congelar la convocatoria de la veintisiete promoción coherencia señor martínez o realmente no es esto lo que les preocupa voy terminando señora presidenta pedían que la policía judicial actúe con dependencia funcional y orgánica permanente de los juzgados de instrucción

hay que recordarle al señor martínez que la policía judicial no está regulada

si lo que quieren es modificar esto lo que tienen que hacer es una ley orgánica plantearlo

planteábamos que se siga cumpliendo con lo regulado en la sección tercero del título cuarto de la ley vasca

finalmente también respecto a las a ver aquí

parece que les pica o les molesta lo que les estoy diciendo bukatu mesedez

buenas tardes señoras consejeras señorías yo tengo que confesarles sobre todo a esta hora de la tarde que me siento bastante reconfortado por el tono empleado en este debate fíjense de lo que estamos hablando

sobre la misma materia hace no demasiado tiempo y esto es algo positivo porque

del recordatorio que el proceso no es una condena sino que el proceso está lleno de garantías plagado de garantías y que así debe de ser en un estado democrático y de derecho como es el nuestro y que es la condena la que

hipotéticamente un tribunal o un juez y es la que después de la cual

pero que la condena en un estado democrático y de derecho y permítanme que se lo recuerde aunque otros ya lo han recordado pero

la condena la dictan los jueces y en cualquier caso los tribunales

de una manera retórica hay corrupción en euskadi se respondía él también porque

preguntarte y responderte por supuesto y nosotros creemos que evidentemente que sí

o lo grave siendo esto grave o lo relevante no es que exista la corrupción porque

ostenta determinado ejercicio de poder sino que lo verdaderamente relevante es cómo reaccionamos ante la corrupción o cómo introducimos elementos de control o de prevención también

no se produzca o en caso de producirse cómo se reacciona y cómo

en esta cámara con aquella proposición no de ley y la pregunta es si desde entonces han cambiado cosas nosotros creemos si hacemos un análisis sosegado y sereno creemos que sí han cambiado cosas desde el año dos mil catorce que sí se ha legislado

para hacer más difícil que esas grietas que el estado democrático de derecho tiene sean aprovechadas por quienes quieren aprovecharse

los poderes públicos las instituciones en reaccionan para tapar esas grietas o para achicar esos espacios para que el corrupto el caradura el jeta

en el congresos de los diputados más de setenta iniciativas legislativas aprobadas la pasada legislatura para intentar evitar y ponérselo difícil a los corruptos se ha reformado la ley de enjuiciamiento criminal

se ha reformado el código penal endureciendo las penas también para los corruptos incluso introduciendo un elemento que en españa no existía y que hoy sí existe por

de los individuos se han hecho cosas yo tengo la sensación nosotros creemos que en buena medida se han interpretado que hay que reaccionar y que hay que ponerlo más complicado yo creo que en este sentido si hacemos un análisis sereno yo creo que podremos compartir esto se han hecho cosas en euskadi yo creo que también se han hecho cosas en

sobre materias de transparencia para ponérselo también

no del todo que podemos hacer más es decir creemos que nos podemos dotar más herramientas para mejorar no solo la prevención sino también

de la enmienda de transacción a la que han llegado el partido socialista y el partido nacionalista vasco fundamentalmente porque compartimos que es oportuno tener una fiscalía delegada para delitos económicos en la comunidad autónoma del país vasco ya lo pedimos en el año dos mil catorce

pero no es menos cierto también que si hoy alguien ha podido

en la comunidad autónoma vasca es porque el estado de derecho funciona y reacciona porque al corrupto se le termina cazando

proporciona una responsabilidad política se le caza

y si hoy a flotado en esta cámara la enumeración como les digo de personas y de casos

por lo menos a un proceso con garantías a quien presuntamente ha sido corrupto

o será absuelto o será un corrupto declarado pero sí creemos que es bueno

si existiera también ese fiscal delegado para delitos económicos en la comunidad autónoma vasca y también creemos

que la ertzaintza tiene que ser una policía verdaderamente integral y esto no solo lo proporciona la ley

igual que en otras muchas materias también en los delitos económicos también

una policía de la que nos pudiéramos sentir orgullosos y hoy todavía no existe eso y son otras policías son otras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado las que funcionan con contundencia y con rotundidad y es algo que nos enorgullece

por su acción y por sus resultados de esta lucha contra la corrupción votaremos por lo tanto a favor de la enmienda a la que han llegado el partido

y rechazaremos la enmienda de transacción acordada entre bildu y entre podemos fundamentalmente por un motivo y es que discrépamos porque nos parece incompatible que un estado de derecho con las garantías mínimas que debe proporcionar a los ciudadanos el punto seis punto uno lo enumero así para

no creemos en listas no creemos en censos públicos nos parece absolutamente incompatible en un estado de derecho

bueno me decía la señora castelo que no me he dirigido a ella pues no

por la experiencia y por la cuenta que me trae ya entiendo que

va a hacer ir por la misma dirección que con dirigirme al socio mayoritario es suficiente

con el discurso que usted ha lanzado aquí ha quedado demostrado

ha quedado demostrado porque parecía que sus argumentos estaban directamente sacados de sabin etxea no me mires con esa cara porque es verdad

no nos encontramos con ningún tipo de influencia política en su discurso porque al fin y al cabo la enmienda que han presentado con el partido nacionalista vasco lo que dice es seguir haciendo lo mismo y seguir haciendo más de lo mismo y estoy seguro de que si estuviéramos en la legislatura pasada ustedes hubieran aceptado nuestra enmiendo

qué es lo que han planteado y aquí otra cosa le voy a decir la memoria que yo he leído es la misma a la que usted se ha referido la memoria de dos mil quince publicada en dos mil dieciséis en los cuales las demandas que ha hablado fiscalía de donostia oficina de bilbao fiscalía de gipuzkoa aparecen en la página doce

cuestiones que yo estaba planteando antes

estamos cansados de este tono de dar lecciones antes parecía que el señor andueza había inventado la pólvora y nos ha trasladado

es la misma y por último respecto a lo de mañana nervioso yo no estoy en ningún caso

que es la que ha utilizado su cargo en la mesa de la comisión para tomar una decisión política antirreglamentaria

primera cuestión fíjese que yo no he hablado de un aumento de la plantilla de la ertzaintza yo he hablado de un aumento de las personas que se dedican a los delitos económicos en la ertzaintza

no hay veinticinco personas en la unidad que se dedican a los delitos económicos veinticinco

por ciento del cuerpo de la ertzaintza dedicado a esto y no en exclusiva y no en exclusiva

eso se puede cambiar sí porque me gustaría saber en los tiempos que corren

cuando tenemos a veinticinco dedicándose a los delitos económicos y cuando he planteado antes lo de la ope que como ya ha quedado claro que se va a hacer que por lo menos estudien los perfiles que se van a llevar a cabo en la ertzaintza si se van a aumentar el número

podríamos atacar también este tipo de delitos y yo sé que a ustedes les gusta mucho hablar de la presunción de inocencia porque ya lo demostró el señor egibar cuando abrazó al señor de miguel en este mismo parlamento

y también sé que se reúnen su consejera de justicia con la fiscalía ya lo sé

memoria anual que yo he anunciado antes pero es que faltaría más que no se reunieran

lo gestionan todo algunos de los alcaldes y por último sí que me gustaría hacer otro apunte una vez más aquí se va a dar un acuerdo entre pnv pse y pp y yo algo les voy a decir la corrupción

y con la que tanto comparan la situación de euskadi es la corrupción que principalmente hace el partido popular y cuando uno pacta con el partido popular

desde luego es que va por mal camino porque están ustedes pactando una enmienda transaccional en la que el partido popular se siente

cuando todos los grupos de la cámara han abandonado la cámara porque la comisión de investigación que se está dando es una pantomima menos el pp y ustedes

sobre todo contar que traer hoy esta iniciativa al parlamento es algo que es obligado

la ciudadanía la ciudadanía vasca parlamento vasco y

como decía el deusto barómetro un cuarenta por ciento piensa que el gobierno vasco tiene corrupción

de la corrupción negra de la gris y de la blanca hoy sobre todo hemos puesto el foco sobre todo

a malversación de fondos públicos o a la financiación irregular de los partidos políticos

la blanca que se refiere por ejemplo al enchufismo y a las redes clientelares de estas hay en euskadi y mucho pero sobre todo es una cuestión de responsabilidad política lo hemos planteado tratando de buscar acuerdos aunque el señor zorrilla diga que no

lo hemos hecho con una mano tendida que han rechazado por partida doble sin respuesta sin respuesta

lo hemos hecho pidiendo una comparecencia para hacer un diagnóstico de la extensión de la corrupción en euskadi que la han rechazado

porque es una cuestión de justicia social la corrupción no solo está comprobado científicamente que limita el desarrollo económico es que además genera desigualdad social

para nosotras esto no es anecdótico va más allá

es hacer de euskadi no su falso oasis vasco sino una tierra de oportunidades

señor zorrilla

en esta segunda réplica creo que además así se lo habían comunicado pero es que de verdad creo que no ha entendido nada de la primera intervención y es que creo que estaba usted más preocupado del sprint discursivo al que nos ha sometido que incluso no le ha cabido en los tres minutos añadidos que le ha dado la señora presidenta

en estar atento a lo que le estaba intentando

yo en eso me he basado para precisamente hacer esa primera lectura de lo que es corrupción eta transparency internationalek

hori dela korrupzioaren definizioa es decir el uso del poder público para la consecución de beneficios no legítimos por lo tanto es verdad he hecho una relación

porque había triquiñuelas hay chanchulleos hay casos condenatorios hay imputaciones o en términos legales ahora mismo investigados es lo correcto creo pero de todas maneras creo saber

y si no me corrige porque puede haber recursos no resueltos en dichos casos o nuevos datos que reabran

en las investigaciones pero lo que realmente me ha preocupado es el tema de que haya tildado mis palabras de deshonestas y de irresponsable y

y ante esto me gustaría que usted luego en su segundo turno de réplica me podría decir a continuación voy a pasar a leer

y que usted me diga si considera que son honestas y responsables también estas declaraciones si las comparte y si pueden ser así

afecta especialmente a los partidos que alcanzan el poder y añade y cito textualmente empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero admite

ante lo cual se te abren dos posibilidades la primera exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio total del encargo

o te encargo la fabricación y estos uniformes o te asigno la contrata de tal o de cual

y la segunda y cito textualmente tu atribuyes estos trabajos conforme a la ley por las vías de la adjudicación establecidas

con mucha dificultad y así lo recoge en su biografía el señor xabier arzalluz y añade finalmente tengo el convencimiento de que todos los partidos importantes

especialmente en una entrevista en dos mil quince el exdirigente del pnv y ex portavoz del ejecutivo vasco el señor joseba arregi decía

lo gordo de la corrupción en euskadi todavía no ha aparecido los políticos son humanos como todos los demás y la honestidad se muestra cuando se llega al poder y aparece la posibilidad de poner el cazo incluso

y termino con el actual presidente del tribunal vasco de cuentas públicas que esto ya empieza a ser pues bueno habitual hacer su citación porque esta sí que es realmente preocupante y lo voy a leer textualmente porque a mí esto y perdonen la expresión me parece ya acojonante pueden estar tranquilos porque nunca escribiré mis memorias memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y miserias desgraciadamente habría muchas miserias los que decían una cosa en privado y otra en público los que mentían sabiendo que mentían los que sabían que nosotros teníamos información que no podíamos utilizar y jugaban con ello

los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz

e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer a todos ellos les digo que pueden estar tranquilos honestidad y responsabilidad

no iba a intervenir desde el estrado desde mi asiento pero como me he dejado el boli y no se lo han llevado antes de que vuelva a salir el señor sémper por si acaso me lo voy a llevar

y sus prejuicios han hecho que no se dirija al grupo socialista para tratar este tema

parlamentario que debe ser el que usted con el complejo que tiene con eh bildu que todo lo negocia con ellos y cree que hablar con ellos es lo mismo que hablar con ustedes pero le voy a decir yo

y si lo va a utilizar así que yo creo que lo hace un poco por falta de interés personal en este tema porque usted aquí no venía

a contar lo que ustedes querían contar cuestiones por cierto que cuentan pero que todas han sido enjuiciadas algunas

y otros absueltos ustedes se han preocupado exclusivamente en esta tribuna de eso y yo a ese juego

a su formación casi todo le da un poquito igual y considera que es dar lecciones yo por cierto compañeros no necesito que me aplaudan yo no salgo aquí con tranquilidad digo lo que te tengo que decir no necesito los aplausos de reconforte para nada

cuando se les dice que cojan ustedes la documentación y se la lea porque usted me dice que me lea yo la página doce

para el grupo de trabajo general no para el de corrupción y para el de menores y por eso nos piden dos personas más con el cuerpo de tramitación y también es verdad que lo piden en la fiscalía de bilbao pero es que dice que se tiene que incrementar la plantilla para la sección de violencia contra la mujer entonces no todo vale

pero yo cuando cojo una proposición no de ley y lo que procuro es llegar a un acuerdo para poner en marcha medidas

y ahora en el dos mil diecisiete seguimos pidiendo que se pueda mejorar
que usted no lo entienda lander mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna dígame que yo tengo que abrir los ojos pues igual debería usted aplicarse un poco las frases que dice

que usted ha mencionado y verá la satisfacción de la fiscal de álava cuando habla de determinados casos yo la verdad es que

sociales y que aquí lo que estamos haciendo no es un acuerdo extraño

lo que estamos haciendo es intentar poner medidas desde este parlamento para trabajar contra la corrupción lo que no hacemos es unirnos al partido popular

y eso que por cierto lo hace elkarrekin podemos luego no lo traslada a las redes sociales o sea que la información la verdad es que a mí como también ha dicho el señor lander martínez

lo que ustedes hagan en ese tema a mí lo que me interesa saber lo que va a salir hoy aquí y la verdad es que agradecer al partido popular que vaya a aprobar la enmienda presentada por nosotros para que se solicite nuevamente la creación de un fiscal delegado en asuntos económicos y en lucha contra la corrupción

que se siga con una unidad de policía judicial con una dependencia funcional de jueces tribunales y fiscales

una cuestión que viene en la última de las memorias y es que exclusivamente se abrieron nueve procedimientos por delitos de malversación de fondos públicos

frente a veintisiete del ejercicio anterior y que el descenso fue todavía mayor en araba donde se pasaron

algo se estará haciendo algo estaremos haciendo para que todo esto vaya en un descenso continuado

yo lo que quería poner de manifiesto y creo que he sido bastante claro

podemos elkarrekin podemos y por otro no es coherente con lo que luego cuando se puede hacer con los hechos que plantean

les importa decía que

del número y de la formación ya sabemos lo que piensan ustedes sobre los cuerpos de policía también sobre la ertzaintza lo han demostrado con hechos y la formación si se reduce

no se puede exigir más formación esto es como la botella medio llena medio vacía dicen al acuerdo de pnv psoe con el partido popular lo mismo podríamos decir del acuerdo que tienen ustedes tácito con euskal herria bildu no lo sé la propuesta me dice que han hecho una propuesta y que no hemos contestado más que un no

no merece la pena ni seguir hablando no obstante

respecto a lo que decía el señor estarrona hablaba de honestidad

en primer lugar vuelvo a incidir hablar de corrupción política en euskadi y hablar de casos que han sido archivados definitivamente por la justicia muchos de ellos

es poco honesto por no decir nada honesto en segundo lugar hablar de palabra poner aquí palabras de una persona que está fallecida y que no puede defenderse es

honesto no sé si existe la palabra inhonesto pero no honesto

cuántas sentencias condenatorias ha habido isiltasuna mesedez yo sí que conozco sentencias condenatorias y muchas sin derecho a la defensa
el asesinato del ingeniero ryan en lemoniz el sargento goikoetxea

aquí sí que hubo sentencia condenatoria y ejecución por lo tanto ustedes no nos puede hablar de corrupción dar lecciones intentar dar lecciones de corrupción al partido nacionalista vasco cuando la mayor corrupción es la ética
y moral y todavía tienen que dar muchos pasos para ello a ver isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez termino con podemos

me he molestado en hacer este trabajo para poner en evidencia sus planteamientos pero está claro que podemos cuál era

les ha dado unos resultados más o menos razonables a euskadi que

y he de decirle algo que ya sabe y por eso presenta esta iniciativa que podemos es fruto o consecuencia de la corrupción política

algunos de los miembros que conforman elkarrekin podemos podemos

indignación ciudadana ante ello y está claro que sin ella no pueden vivir porque les tiene que servir para retroalimentarse sin ello no pueden subsistir y termino en pasadas legislaturas eh bildu upyd y en menor medida el partido popular intentaron criminalizar la política

electorales a la vista están los resultados condenas firmes cuántas pero sí muchas penas de banquillo injustas y el pnv no olvida el pnv no olvida y electoralmente

sea básicamente fruto de la corrupción

hay probablemente otros factores que lo explican y una incertidumbre general hay una crisis económica que provoca esa incertidumbre generalizada pero que es verdad que azuza el sentimiento de corrupción la corrupción que existente para

sino que cuanto más arda el bosque mejor pero sí le voy a decir una cosa al señor martínez para

usted ha utilizado un argumento contra el partido nacionalista vasco aprovechando que el partido popular pasaba por aquí

que fíjese qué texto han llegado a acordar ustedes entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista que hasta el partido popular

yo le puedo asegurar que el patrimonio más importante que tenemos los nueve parlamentarios que nos sentamos en esta cámara el patrimonio más importante que tenemos

y el que no voy a permitir que nadie lo manche es el de la honradez y la honestidad honradez y honestidad además forjada y labrada en las circunstancias más difíciles como usted bien sabe

y honradez a través de una trayectoria también que ha demostrado una vocación de servicio público a prueba de bombas y esto es en sentido literal

con lo cual ya entramos en una esquizofrenia política que yo no sé quién tiene razón entonces para no intentar volvernos locos todos usted se sienta para hablar conmigo para intentar que votemos su iniciativa lo cual me parece razonable es más le he dicho si me parece razonable lo que planteáis en el texto usted no ha salido corriendo ha dicho bueno que bien y me dice usted me advierte bueno pero lo vamos a pactar con los de bildu o sea que puede salir otra cosa como diciendo bueno

y al ver el texto que ustedes han acordado con bildu en el que se habla de un censo que

le he dicho hombre esto no lo podemos aprobar porque es escasamente democrático

no rompamos no alteremos los términos de diálogo y de comunicación entre las formaciones políticas y las reglas mínimas de conversación y de contacto entre los partidos políticos porque si rompemos y hacemos saltar eso por lo aires de ahí vamos a poder construir pocas cosas edificantes

con la que se dirigen al partido nacionalista vasco y ese miedo reverencial que les tienen no se lo voy a achacar no me parece oye cada uno pues tiene sus miedos y cada uno tiene

pero mantengamos el debate al menos en esta cámara en términos de equilibrio y racionalidad y por eso comenzaba mi primera intervención y no era irónico valorando y alabando

a otro poder pero ese tono y ese ajuste al derecho y a la presunción de inocencia

y cuando alguien sea condenado y cuando un partido político reaccione se comporte de una manera equivocada o no ajustada precisamente a los cánones mínimos de la ética política denunciémoslo con rotundidad y denunciemos al corrupto una vez que haya sido condenado pero mientras tanto valoremos

como les decía en alguna otra ocasión el procedimiento la acusación no es la condena

y la acusación está jalonado de garantías que se ofrece y que el estado y que el sistema proporciona a cualquier ciudadano aunque los delitos que pesen sobre él o las acusaciones que pesen sobre él sean las más graves porque si no estaríamos no en un estado democrático y de derecho sino en la ley de la selva y yo le puedo asegurar que aunque algunos quieran

el parlamento vasco hace suya la declaración parlamentario de roma aprobada en la conferencia internación de parlamentarios parlamentarias ge siete ge veinte de

la declaración íntegra está disponible en la página web del parlamento vasco hamaika orri ditu beraz nahi duenak irakurri dezala